buenos días señora presidenta señorías señora consejera puedo asegurar que cada día

y los más de quinientos millónes de europeos asumimos que la comida que encontramos en los mercados en el comedor de la empresa en la escuela

es segura para el consumo sobre esto sobre la seguridad alimentaria versa la interpelación que presentamos o que presento hoy en nombre del grupo popular señora consejera poco importa el etiquetado o la comercialización la innovación e incluso la nutrición si el alimento no es seguro la enfermedad de las vacas locas y la crisis de la biosina de la década de los noventa impulsó

creando posteriormente la agencia europea de la seguridad alimentaria desde entonces se han elaborado políticas y reglamentos alrededor de setenta los que existen en este momento muy exigentes para evaluar y comunicar los riesgos riesgos están ahí y cada cierto tiempo saltan nuevas crisis de alimentos óptimas condiciones saludables se encienden las alarmas y una vez pasadas nos volvemos a relajar y nuevamente ante una nueva crisis

ayer mismo podíamos leer un artículo que decía que las verduras

es evidente que el proceso de producción de alimentos es complejo y que es necesario abordar la seguridad alimentaría con un planteamiento global que comprenda toda la cadena

desde la explotación a la mesa con un objetivo la protección de la salud de la población en esta protección efectiva

se debe considerar todas las perspectivas posibles de la alimentación la sanidad el bienestar de los animales la sanidad vegetal el medio ambiente

y la política de consumo se ha demostrado que la cadena alimentaria es aún y que requiere de la máxima atención son las administraciones competentes en cada estado miembro de la unión europea las encargadas de cumplir con la legislación europea

respuesta apropiada a los nuevos retos y exigencias para garantizar el suministro de alimentos aptos y seguros para el consumo humano y señora consejera

la comunidad autónoma vasca no y sorprende que para esta legislatura tampoco figure en su calendario legislativo una ley sobre seguridad alimentaria y es por lo que le hemos planteado desde el grupo popular esta interpelación la realidad es que el partido nacionalista y sus gobiernos han puesto de manifiesto en esta cámara que su interés a la hora de legislar sobre seguridad alimentaria

en el año dos mil ocho esta parlamentaria en nombre del grupo popular vasco

a que elaborase una ley de seguridad alimentaria y el gobierno nacionalista dijo no el argumento era genial ya se había creado safe consortium asociación europea para la seguridad alimentaria

y no era necesario hacer nada más ni plenas competencias ni autogobierno ni estatuto parecido balones fuera pero hete aquí que llegan las elecciones del dos mil nueve sorpresa no gobierna el partido nacionalista

que presenta el partido nacionalista en la oposición pues que

una proposición no de ley instando al gobierno que elabore un proyecto de ley de seguridad alimentaría bueno han cambiado de criterio no está mal

el partido nacionalista ha visto la necesidad de elaborar una ley de seguridad alimentaría

esta iniciativa con una modificación en la que se sumaba salud nos pareció bien a todos los grupos de la cámara también al partido nacionalista

elaboró un proyecto un borrador de proyecto que conocemos muy bien en esta cámara porque el partido nacionalista vasco en la oposición

y pidió ese borrador y el gobierno se lo entregó y lo tenemos como documentación en esta cámara

nuevo gobierno nacionalista y la seguridad alimentaría desaparece del calendario legislativo y tampoco aparece tiene ninguna mención en la planificación de trabajo para la legislatura no existe una sola palabra que haga referencia a

entenderán por qué decía que el interés del partido nacionalista sobre la necesidad de elaborar un proyecto de ley sobre seguridad alimentaria es intermitente

si gobierno no me interesa si no gobierno sí y señora consejera para el partido popular la seguridad alimentaria no es negociable ahora no es singular ver cómo los distintos gobierno nacionalistas hacen ostentación de sus plenas competencias que le son otorgadas por el estatuto de autonomía

en política agrícola común sabiendo que es una competencia del estado del gobierno central que lo han dicho los tribunales que lo han dicho los tribunales señora consejera así es

desconocemos cuál es el interés del gobierno en este tema

este aspecto su departamento tiene una fundación asignada que está adscrita al departamento de desarrollo económico y competitividad

en la seguridad alimentaria y bueno ha añadido una coletilla nueva

y quisiera que me explicase cuál es ese nuevo modelo porque es una cuña nueva

y no sabemos cuál es también nos gustaría que nos explicase y espero su respuesta muchas gracias

eskerrik asko presidente andrea para el partido nacionalista vasco y para este gobierno y otros

la seguridad alimentaria no ha sido nunca un juego y no ha sido nunca intermitente y usted lo sabe

si el partido popular tanto interés ha tenido durante tanto tiempo en elaborar un proyecto de ley han tenido cuatro años sustentando un gobierno que hizo un borrador por qué no lo terminó

pero bueno efectivamente tal como se señala en esta interpelación nuestra comunidad carece de esa ley específica no obstante eso no quiere decir

desde sus inicios tanto el gobierno como diputaciones forales y ayuntamientos han realizado una labor continua en defensa de la calidad y seguridad de nuestros alimentos y desde luego en pocos lugares se podrá decir como se puede decir en euskadi que no ha existido ninguna crisis de ese tipo que no se haya controlado desde el primer instante en euskadi la competencia en seguridad alimentaria

dentro del gobierno entre los departamentos de salud de desarrollo económico y competitividad de medio ambiente y política territorial y no hay que olvidar que los departamentos de agricultura y desarrollo rural de las diputaciones y los ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes también tienen sus responsabilidades

fundamentalmente la de las vacas locas llevaron a la comisión europea a establecer un cambio en el enfoque de la política de seguridad alimentaria y fruto de todo ello

como documento de referencia en el que se destacan dos principios básicos por una parte la política de seguridad alimentaria

global e integral es decir a lo largo de toda la cadena alimentaria como decía de la granja a la mesa

y no solo en un sector sino en todos los sectores de la misma en segundo lugar el análisis de riesgo a de ser

y se aplica en tres ámbitos por una parte la determinación del riesgo es decir el asesoramiento científico para llegar a esa determinación de riesgo

a través de la reglamentación y control correspondiente y la comunicación sobre ese riesgo e inspirándose en estos principios ya en el año dos mil uno es decir un año después de ese libro blanco el entonces departamento de agricultura pesca y alimentación del gobierno vasco puso en marcha la fundación elika elikadura segurtasuneko euskal fundazioa fundación vasca para la seguridad agroalimentaria

en estrecha colaboración entre los departamentos competentes con el gobierno vasco evidentemente con las diputaciones forales y los ayuntamientos

es decir todo lo contrario de esa intermitencia continuamente se lleva un análisis de riesgos potenciales que pivotan sobre

un comité científico independiente multidisciplinar

bien biológico por bacterias virus parásitos y demás o bien químico

hidrocarburos metales pesado u otros además un comité gestor compuesto por representantes políticos de las administraciones competentes que son los que en base a los dictámenes científicos plantean las medidas a tomar y desde el año dos mil diez existe además un comité técnico operativo

que por su proximidad con los operadores de la cadena alimentaria son los encargados de la detección de esos potenciales riesgos que comunican al comité científico y se analizan desde un inicio

de la que desde luego no nos enteramos ninguno se lleva a cabo de forma continuada y son unas prácticas que evitan que nos pongamos en riesgo en cualquier momento

se ponen en marcha los planes de control de la cadena alimentaria que son implementados por el gobierno vasco las diputaciones y los ayuntamientos y que son los que abarcan los previamente definidos como de la granja a la mesa abarcan eslabones de la cadena

todos ellos y constituyen una herramienta preventiva de primer orden la coordinación de los mismos se lleva a cabo

en conjunto con el departamento de salud contando en el caso del departamento que dirijo con el apoyo técnico de la fundación elika esta labor de prevención

se ve reforzada por el trabajo continuo de asesoramiento técnico y científico en seguridad alimentaria que elika presta a todos los operadores de la misma desde el año dos mil uno que va perfeccionando

y que como decía va dotándose de nuevas herramientas para garantizar la seguridad analiza todos los diferentes grupos focales desde la agricultura ganadería

alimentación animal pesca y también se hace una labor continuada de promoción de la investigación en seguridad alimentaria

contando para ello con todos los centros de investigación de euskadi

con operadores y centros de investigación coordinada por elika no es algo puntual desde hace varios años las nuevas tecnologías nos permiten trabajar de forma continuada

es decir de forma inmediata y constructiva además el área de vigilancia tecnológica de elika

y se encarga de dicha labor de gestión del conocimiento en red para todos los agentes de la cadena alimentaria

el carácter amplio de lo que supone el concepto de seguridad alimentaria el fin último es la salud de todos nosotros de todos los consumidores pero no solo

la suficiencia en el abastecimiento también es seguridad alimentaria y el bienestar de los animales y el cultivo responsable de nuestras materias primas también

en seguridad tal y como he comentado previamente se encuentre distribuida y repartida entre instituciones y departamentos de una misma institución facilitando a través de elika la máxima coordinación entre todos los hechos avalan sin ningún lugar a dudas la trayectoria ejemplar que se ha llevado en seguridad alimentaria en lo que a euskadi respecta ello no significa que no sean necesarias mejoras

en una mejora continua en el marco jurídico como en labores de implementación de todas las técnicas desarrolladas

en definitiva en todos y cada uno de los aspectos que se están trabajando sin embargo he de decir que en lo referente a la elaboración de un proyecto de ley de seguridad alimentaria es preciso contar

departamento competente en esta área ya que estamos hablando en definitiva de aspectos de salud pública de salvaguardar la salud pública sin dejar de lado la opinión de las diputaciones forales cuyo papel también es determinante

en un continuo diálogo entre todos los agentes se tomará la decisión de si en este momento euskadi necesita ese marco regulatorio propio en forma de ley o si a través del trabajo que se está realizando en este momento con unas actividades de mejora

como le decía el gobierno no sabe qué hacer ante la seguridad alimentaria el partido nacionalista vasco tampoco tiene criterio en este momento lo va a dejar a los técnicos me parece muy oportuno

que es una competencia compartida el noventa por ciento por no

del volumen que gestiona su departamento es de gestión compartida

ustedes ese departamento y el partido nacionalista vasco

múltiples leyes o sea que esta especialmente

eso está claro señora consejera

esa asociación que referencia por lo menos aquí quedó justificado así para el partido nacionalista vasco como

referente para actuaciones en seguridad alimentaria que yo no digo que no sea

ha elaborado un documento con treinta y cinco expertos donde se proponen cinco áreas de trabajo en las que profundizar

debe formar parte de la agenda científica y de los programas económicos de los gobiernos lo que podemos decir es que en su gobierno

esta iniciativa por lo menos ha puesto de manifiesto que su departamento se entere que tenía una responsabilidad de seguridad alimentaria porque hasta hoy

nosotros entendemos que es necesario elaborar una ley entendemos que es necesario y así lo propusimos en el año dos mil ocho usted me ha contado aquí lo que se hace en seguridad alimentaria en nuestra comunidad autónoma y efectivamente lo conocemos perfectamente

criterio en sí elaborar una ley o no ustedes el gobierno tienen

de salud y seguridad alimentaria lo van a destruir

ese trabajo porque en sus actuaciones en el departamento hasta el día de hoy lo que ha hecho es plena continuidad de los decretos que ya estaban elaborados por el anterior gobierno volverlos a reeditar por lo tanto tampoco sería mayor problema para usted retomar ese documento y profundizar en él si en algo hay que mejorar pero el documento está elaborado

o sea los trabajos están avanzados si le interesa me gustaría saber si lo conoce si le parece oportuno si ve pegas

gustaría conocer porque es verdad todos los grupos de esta cámara aprobamos aquella iniciativa todos fuimos conscientes de que había una necesidad y que se pusiera el gobierno a elaborar ese documento no sé si ustedes lo van a destruir y van a elaborar uno nuevo o vamos a esperar a que sabemos quién nos diga si lo tenemos que hacer hombre un partido de gobierno y un gobierno

que me diga usted que ya veré que ya me dirán

eso es un gobierno me gustaría que me aclarase

eskerrik asko señora lópez de ocariz para no saber qué hacer hacemos bastantes cosas creo en seguridad alimentaria

en cualquier caso lo que no me gustaría es que hiciera usted demagogia con este tema la seguridad alimentaria se ha cuidado y se cuida al cien por ciento por tanto demagogias las justitas

la ley no es más que un mero instrumento para llevar a cabo una serie de políticas ahora bien las políticas se están llevando a cabo otra cosa es que como usted dice que en gestión compartida hay que analizar si esa ley está bien preparada

lo valoraremos políticamente entre todos los implicados pero recuerde por favor que la ley es solo un instrumento y de hecho de facto se está llevando una seguridad alimentaria y

agenda científica y qué son nuestros centros tecnológicos neiker y azti por cierto reconocidos a nivel mundial como no existen otros qué hacen si no hacen agenda científica en seguridad

en qué se dedican y debe usted leerme el pensamiento pero no sé en que zona del cerebro me la lee porque para no saber que los tengo yo tengo una serie de centros tecnológicos sé perfectamente que tengo la fundación elika sé como funcionan trabajamos con ella todos los días me debe usted leer el pensamiento raro o me debe leer una zona en la que no están ahí los centros tecnológicos no me haga demagogia

vamos a trabajar en serio con aspectos de seguridad alimentaria vamos a trabajar con nuestros centros tecnológicos y con la fundación elika con las diputaciones con los departamentos correspondientes del gobierno y vamos a hacer lo que hay que hacer pero por favor

repito la gestión que se ha hecho en seguridad alimentaria ha sido ejemplar y nos lo reconocen en todas partes eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias presidenta sigamos hablando de la

antes hemos hablado de corrupción y hemos denunciado que este gobierno no hace todo lo necesario para acabar

y ahora en la euskadi del siglo veintiuno en esta euskadi moderna sostenible solidaria que algunos nos quieren vender

inseguridad laboral de explotación laboral de condiciones de semiesclavitud

podemos hablar todo esto y vamos a dirigirnos al consejero correspondiente efectivamente hemos tenido conocimiento a través de un medio de comunicación

una de las obras emblemáticas que se están desarrollando en nuestra comunidad se están realizando jornadas de doce horas siete días a la semana por novecientos setenta euros se reproduce en la citada información documentos que acreditan que

en condiciones de semiesclavitud en fin señor consejero qué sabe usted de esto qué medidas se han tomado para erradicar estas malas prácticas

qué se va a hacer de ahora en adelante su departamento es el responsable de que en euskadi se respeten las condiciones legales y dignas en el desarrollo de cualquier trabajo la construcción del nuevo san mamés ha provocado desde su inicio

que ha sido seguido por todos los medios de comunicación y por gran parte de la sociedad vizcaína y vasca

puede ser efectivamente un motivo para desarrollar malas prácticas por lo que la inspección de trabajo debería haber prestado una mayor atención en nuestra opinión no lo ha hecho se han permitido y se permiten situaciones laborales

se han permitido y se permiten situaciones de esclavitud se invierten muchas más horas de las fijadas por ley no se respetan ni domingos ni festivos los sueldos están por debajo de lo fijado en los convenios las horas extras no aparecen reflejadas en las nóminas lo que significa que o bien no son abonadas

y como consecuencia de ello se está produciendo fraude fiscal fraude fiscal del que solemos debatir abundantemente en muchas ocasiones en esta cámara

de esclavitud en fin parece ser que el gobierno vasco dice que no hay irregularidades así hemos leído en la prensa pero

en fin qué más tiene que pasar para que los poderes públicos tomen cartas en el asunto y acaben con la inseguridad laboral con los accidentes y con estas situaciones que realmente son injustificables en fin atendiendo a esta situación interpelamos al consejero para conocer qué medidas tiene previsto adoptar para erradicar

hayan existido y existan a día de hoy gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko aburto jaunak dauka hitza

esclavitud malas prácticas hay que hacer más hemos conocido por los medios de comunicación señor maneiro

ni un solo dato yo creo que ante cuestiones de tanto calado ante cuestiones que afectan a la seguridad de personas yo creo que es bueno hablar con mayor rigor por contestarle

hemos hecho lo mismo que en el resto de actividades laborales en las que tenemos conocimiento de que se pueda estar produciendo en su caso una vulneración

intervenir desde la inspección de trabajo usted ha manifestado la inspección de trabajo no ha hecho nada la inspección de trabajo lleva interviniendo

la inspección de trabajo tiene asignada entre otras la función de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales

jurídico técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención aunque no tuvieran la calificación directa en su caso de normativa laboral

su función primordial es la vigilancia en el cumplimiento de las normas de orden social adoptando en su caso las medidas necesarias para exigir las responsabilidades que se deriven la ley cuarenta y dos barra mil novecientos noventa y siete de catorce de noviembre ordenadora de inspección de trabajo y seguridad social

señalando que se actuará de oficio siempre como consecuencia de orden superior a petición razonada de otros órganos por propia iniciativa o en virtud de denuncia todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen en consecuencia

a sus dimensiones técnicas y al volumen de medios humanos y materiales empleados en la misma la inspección ha aplicado especial rigurosidad en sus actuaciones

y a iniciativa propia recavando en su caso la documentación oportuna de las diferentes empresas le voy a destacar algunas de las actuaciones desde septiembre de dos mil once se gira visita

tanto en la fase de cimentaciones como en la fase de movimiento de tierras se realizaron actuaciones sobre unas treinta empresas ese día

ha señalado las inspecciones a mi juicio en cambio son exhaustivas se recaba información relativa a las siguientes cuestiones

acta de designación de coordinador de seguridad y salud acta de cada reunión de coordinación anotaciones realizadas en el libro de incidencias carta de adhesión al plan de seguridad de la obra nombramiento de un responsable de seguridad

formación en prevención de los trabajadores información de los riesgos del puesto de trabajo

justificante de entrega de equipos personales de prevención a cada trabajador justificante de reconocimiento médico examen de condiciones materiales de trabajo contratos de trabajo recibos de pago de salarios justificantes de encontrarse al corriente en el pago de cuotas a la seguridad social consulta a la base de datos de tesorería general

la última de las actuaciones de oficio se realizó el veintiuno de marzo de dos mil trece en la fase de instalaciones mecánicas fase de acabados fase de equipos de elevación

se constataron algunas deficiencias en materia de prevención de riesgos por ello mediante diligencia en el libro de visitas

ley treinta y uno barra noventa y cinco de ocho de noviembre de prevención y con carácter inmediato

procediendo por parte de inspección a verificar dicha subsanación para esto señor maneiro no haría falta acudir a los medios de comunicación sería necesaria con que nos solicite esa documentación oficial asimismo han sido debidamente cumplimentadas

interpuestas por diferentes secciones sindicales por tanto

adoptando a nuestro juicio cuando menos los medios necesarios para velar por el cumplimiento de la normativa legal

tanto en materia laboral como de prevención de riesgos laborales cabe señalar que a pesar de las denuncias realizadas hemos tenido conocimiento

uno de los cuales ha sido calificado como leve acaecido el veinticuatro de mayo de dos mil trece y que se encuentra en curso de investigación y el otro accidente grave

en este último no pudo apreciarse una relación de causalidad entre la producción del daño y la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo creo que se trataba de un infarto

tradicionalmente y debido a los esfuerzos realizados por todos los agentes sociales en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo

podemos decir que ha existido un respeto casi absoluto a la aplicación del convenio de la construcción

del convenio provincial de construcción que señala que al personal trasladado

excepto que el convenio de origen resultará más beneficioso en cómputo anual en cuyo caso se aplicará el de origen en el caso que nos ocupa y como se desprende del libro de subcontratación de las sesenta y siete

existen en estos momentos algunos indicios de que pudieran no estarse aplicando las tablas salariales

en tres de ellas situación que ha sido denunciada y que se encuentra en trámites de comprobación

la denuncia ejercida a través de un medio de comunicación que por cierto

llamamos a ese sindicato para que interpusiera la denuncia donde hay que interponerla eso hicimos desde el departamento la denuncia ejercida insisto de jornadas de doce horas siete días a la semana

y como decía ha motivado que se solicite a la empresa la aportación de documentación asimismo

en compañía de dos subinspectores de empleo giró visita específica con la finalidad de realizar el control de empleo y verificar la existencia de horas extraordinarias en la obra

ratificar o no lo señalado en dicho artículo lo que en estos momentos este consejero ni puede ni debe hacer es exponer en sede parlamentaria los resultados

no tendremos ningún inconveniente en hacerlo cuando la mencionada inspección concluya tengan en cuenta que en aplicación

de la inspección de trabajo y seguridad social aprobado por el real decreto ciento treinta y ocho barra dos mil los funcionarios de la inspección de trabajo debe servir con objetividad los intereses generales

de eficacia y jerarquía con sometimiento pleno a la ley y al derecho y con sujeción a los criterios técnicos y directrices establecidas por las autoridades competentes y deberán guardar secreto respeto de los asuntos que conozcan

de que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones en los términos del artículo doce de la ley ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social

es necesario por tanto esperar al curso de las actuaciones

y actuar con prudencia tal y como nos es indicado desde la propia inspección de trabajo en conclusión la inspección de trabajo

que la normativa le encomienda lo ha realizado con la diligencia necesaria y está realizando su trabajo en estos momentos tanto de oficio

concluya esa investigación no tendremos ningún inconveniente en poner cuantos datos sean precisos al servicio de este parlamento nada más muchas gracias

sí gracias presidenta señor consejero no sé si yo he dicho condiciones de esclavitud creo que he dicho condiciones de semiesclavitud pero en todo caso nos alegra saber que hay una serie de investigaciones abiertas es decir que no vivimos

nos quieren vender es decir se han abierto determinadas investigaciones

investigando determinados asuntos por lo tanto es posible que haya habido una serie de irregularidades y por lo tanto la pregunta es por qué esto

no se han llevado a cabo antes entiendo que lo que usted me ha señalado es que como consecuencia de que determinada información aparece en un medio de comunicación usted llama a un sindicato y como consecuencia de eso se propone la denuncia claro yo creo que hay intentar evitar esto

mucho tiempo antes evitar de que esto efectivamente ocurra la inspección de trabajo quizás he dicho yo que no ha hecho nada creo que no ha hecho lo suficiente y a la vista está estas series de denuncias aparecidas en los medios de comunicación yo he dicho que hemos conocido por los medios de comunicación señor consejero

los datos que yo le he trasladado pues tienen cierta credibilidad que usted aquí pues no ha descartado que se invierten más

que los sueldos están por debajo de lo fijado en el convenio provincial

puede ser que determinados cantidades que deberían aparecer en la nómina no aparece y pueden ser abonadas en negro que quizás las horas extras están pagando fuera de la nómina

de investigaciones abiertas para acabar con una serie de prácticas que creo que se han venido produciendo durante estos meses atrás en esa

pagada con los impuestos de los ciudadanos vascos por lo tanto

y voy terminando algo hay es decir

sí hay algo parece que hay determinadas condiciones laborales no se han cumplido en absoluto parece ser que determinadas condiciones de semiesclavitud

lo hemos leído en un medio de comunicación sino porque tenemos datos precisos sobre la materia o al menos estos datos

es traer este asunto también al parlamento y preguntarle a ello

qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a seguir haciendo para que estas prácticas se erradiquen absolutamente para ello además de la interpelación que nosotros hemos presentado presentaremos la correspondiente moción para

en nuestra comunidad porque es un asunto importante evidentemente ahí estaremos de acuerdo siempre se puede hacer más en este caso es evidente que se puede hacer mucho más y por lo tanto instaremos al departamento instaremos al gobierno instaremos a la inspección de trabajo que

medios necesarios para que estas situaciones no se produzcan seguramente ya se han producido habrá que detectar

responsabilidades y hacer que no sigan ocurriendo en el futuro en todo caso gracias por la respuesta eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko

su labor entre otras cuestiones porque no hablamos de este consejero hablamos de funcionarios y funcionarias

pero le he dicho también que desde septiembre del dos mil once se viene actuando y usted insiste en que actuamos después de que por el periódico

y le voy a poner algunos ejemplos para que cuando interponga la moción lo haga con mayor conocimiento de causa en octubre del dos mil doce

se interviene en una empresa concreta porque existe una denuncia de trabajo en un día festivo

la empresa aporta la documentación necesaria son documentos firmados de mutuo acuerdo entre las partes en los cuales se establece que esas horas se compensarán

y acudiendo a una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco de catorce

se interpreta que con esa sentencia y con la documentación aportada no

lo mismo el veintiséis de octubre del dos mil doce con respecto a otra denuncia por salarios por debajo del convenio

a las partes se aporta la documentación necesaria se establece la lista de personas que trabajaron previa solicitud de la ute

a la sección de medioambiente del ayuntamiento de bilbao en este caso y de la lectura del expediente se concluye también que no se dan las circunstancias para un expediente sancionador exactamente igual ante otra denuncia por salario por debajo de convenio de la documentación aportada

ahí mismo al lado de la obra de san mames

en las mismas fechas hay otro expediente abierto que concluye con sanción por trabajos fuera de convenio por

fuera de convenio porque yo sí considero señor maneiro que trabajar por salarios entre seiscientos y novecientos euros doce horas al día es esclavitud yo lo considero así y creo que no se debiera permitir por lo tanto esta inspección de trabajo va a seguir realizando su labor

este consejero incluso ha ido más allá de lo que seguramente la prudencia requiere y ha dicho que cree que hay

indicios que pueden derivar en que en determinadas empresas en tres en concreto no se estén cumpliendo las condiciones

y traeremos a esta cámara si así se nos requiere cómo concluyen ese expediente en concreto con respecto a esas tres empresas y

seguirá trabajando con el mismo rigor con la misma rigurosidad para que las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad laboral sean cumplidas no solamente en esta obra sino en cualquiera de las

baina ez duzu entzun horretan gogoz aritzen gara con el fin de centrar el debate en relación con el asunto de su interpelación

que a mi modo de entender excede de las competencias del departamento de empleo y políticas sociales

al departamento de empleo y políticas sociales le compete el ámbito de las relaciones laborales

de los y las trabajadoras de euskadi pero tiene limitadas competencias en el régimen de contratación pública aquellas se corresponden a los expedientes de contratación pública que en nuestro ámbito licitemos la inclusión de determinadas condiciones en los pliegos de cláusulas de contratación

territoriales que la configuran el gobierno vasco sus distintos departamentos las diputaciones forales los ayuntamientos mancomunidades consorcios otros organismos públicos que cuentan con dicha capacidad de contratación en consecuencia es a cada órgano contratante quien puede y debe decidir naturalmente dentro del ámbito que marcan las normas de contratación pública qué condiciones exigir a las empresas

por eso como consejero de empleo y políticas sociales no puedo hacer otra cosa

en las que somos competentes y tenemos capacidad de actuación y las cuestiones en las que tenemos capacidad y competencia son dos

muy limitada en este caso como decía en euskera a la viceconsejería de vivienda y la otra relacionada con la inspección de trabajo y la prevención de riesgos laborales

en los pliegos desde hace años y en cumplimiento de un acuerdo alcanzado con los sindicatos insisto desde hace años no desde el nueve de julio del dos mil trece sino que desde hace años se especifica que el departamento dispone de varios técnicos cuya misión consiste en velar porque en cada una de nuestras obras se cumplan las condiciones de trabajo previstas en la legislación y en los convenios correspondientes más aún

se analiza si los plazos de trabajo de esto también hemos estado hablando antes con el señor maneiro y los precios ofertados son coherentes con las horas de trabajo y las condiciones salariales establecidas es decir como contratante

cumplimos con este parlamento con lo acordado en su día en este parlamento en referencia a nuestro papel como responsables de la inspección y la prevención de riesgos

nuestra postura es clara la de exigir el respeto absoluto de los límites que la normativa establece para la garantía de estos derechos

no tengan duda de que una de las grandes preocupaciones del departamento de empleo y políticas sociales y con la que estamos firmemente comprometidos

en el ámbito de la seguridad y salud de las y los trabajadores y de modo especial diría yo en el sector de la construcción precisamente por las características que usted ha comentado en su exposición

a ese objetivo osalan y la inspección de trabajo coincido con usted cuando señala que en determinadas obras

a salarios y jornadas de trabajo y también he dicho antes que hemos sancionado en algunas ocasiones un ejemplo de ello tanto de la existencia de situaciones irregulares como de las actuaciones ejercidas desde

es precisamente lo que hemos relatado en el punto anterior para cumplir nuestro cometido la inspección de trabajo de euskadi realiza de manera periódica durante el transcurso de las obras visitas de control de las condiciones de trabajo y de las previsiones en materia de salud y seguridad se hacen inspecciones

se exigen responsabilidades derivadas de los incumplimientos detectados

la propia contratación de las obras prevé la prohibición de contratar

por incumplimientos muy graves en materia social incluyendo las correspondientes a la prevención de riesgos laborales contribuyen también a alcanzar el citado objetivo las reuniones periódicas que las organizaciones sindicales han venido llevando a cabo con las autoridades laborales de cada uno de los territorios históricos

igualmente en el marco del compromiso por parte de este departamento de incrementar los niveles de seguridad y salud de las y los trabajadores de euskadi

y de la inspección de trabajo en el país vasco para realizar un análisis pormenorizado de los últimos accidentes laborales ocurridos en esta comunidad

y acciones concretas que contribuyan de manera efectiva a aumentar dichos niveles de seguridad y salud en los centros de trabajo en cualquier caso

y salud de las y los trabajadores es una tarea en la que deben debemos participar la totalidad de los agentes implicados promotores

servicios de prevención organizaciones sindicales trabajadores y trabajadoras y en ese camino no tengan ninguna duda nos podemos encontrar

me quedo muy como estaba vaya muy buenas palabras

pero lo que no entendemos todavía a día de hoy es por qué realmente no se está cumpliendo y la interpelación venía a decir que por qué si desde el año

una proposición no de ley por ejemplo entre otras cuestiones por qué ahora se ponen en marcha ese tipo con osalan para verificar

sí entiendo que en cierta medida no le haya satisfecho mi intervención porque gran parte de los datos los he dado en la intervención anterior y creo que por respeto al resto de los parlamentarios no había que repetirlos en todo caso

de gipuzkoa artículos cinco seis siete y ocho de la misma dice que deben contemplarse en los pliegos de las condiciones

desde el año dos mil cinco le animo a que haga una comparación y verá como

que los pliegos de visesa van más allá en cuanto a las condiciones esenciales del contratista

laboral y preventiva en lo que hace referencia a este departamento como contratante

le diré que además en el ámbito concreto de la construcción se han hecho campañas desde la inspección de trabajo con las condiciones materiales de seguridad con las obligaciones de la ley treinta y dos barra dos mil seis

con el seguimiento de obras de rehabilitación con el control de prevención de trabajadores transaccionales en los cuales se han establecido sanciones con las actuaciones en obras públicas y que no es que ahora solamente hemos constituido este grupo de trabajo por un momento puntual

de incidencia ha bajado del dos mil doce al dos mil trece se ha producido en los meses de agosto y septiembre una situación que creo que es preocupante por eso hemos establecido ese grupo sino que ya desde el año dos mil diez existe una comisión de seguimiento obras públicas en bizkaia comisión que establece sus actas

en cada uno de los tres territorios que hace sus actas y sus trabajos por lo tanto yo creo que hacemos nuestro trabajo de manera adecuada creo que la investigación

de la inspección de trabajo como decía antes voy a repetirlo brevemente

barria hay inspecciones abiertas en este momento a tres empresas por indicios de incumplimiento y como he trasladado antes

en traer cual es la conclusión de la misma para finalizar recientemente

no hay que ir tan lejos en este parlamento en julio

aprobó una proposición no de ley cuyo punto cuarto decía instar al gobierno vasco a que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos que vaya a licitar se valore positivamente el hecho de que las condiciones laborales del personal de las empresas concurrentes estén reguladas sobre la base de un convenio colectivo me imagino que sabe cual fue el voto de bildu en ese caso por si no lo sabe se lo voy a recordar se abstuvieron hitzetik ekintzetara eskerrik asko

volvemos a interesarnos los socialistas por la mesa de diálogo social en el periodo de sesiones anterior

algunas preguntas para respuesta por escrito para conocer realmente la apuesta del gobierno vasco en esta materia posteriormente presentamos una proposición no de ley que el cinco de mayo se aprobó instando al gobierno a reabrir dicha mesa

mandato que no se llegó a cumplir finalizando el periodo de sesiones

al consejero cuestiones relativas a ese incumplimiento y se nos dijo que se trataría de reabrir esa mesa con posterioridad al siete de julio

que por una parte se cuestionaba la idoneidad de convocar la mesa aduciendo que

claro eso lo conecto con las declaraciones que hacía el secretario general del principal sindicato vasco a primeros de año

que ellos luchaban por obligar a la política a aceptar sus reivindicaciones que se insertan como es sabido en la conocida estrategia de confrontación pues parece evidente que dicha estrategia de confrontación ha hecho claudicar a este gobierno

en cuanto a lo que es impulsar políticas de diálogo y concertación esto es al menos lo que parece porque a día de hoy

de que este foro de encuentro de vaya a convocar no tenemos noticia alguna hasta ahora no se ha hecho

qué acción de gobierno hay para restablecer el diálogo social en estas circunstancias el paro está aumentando en euskadi ahora a un ritmo mayor que en españa y el mensaje

que la situación es preocupante pero que los datos van mejorando y sitúa en dos mil catorce

cuando hasta hace poco era al revés no sé cómo se puede decir que los datos están mejorando no concuerda tampoco con sus postulados de gobierno de que su principal meta es la cohesión social y ceden terreno ceden pie ante

que dicho sea de paso tampoco son tales porque verdaderamente la confrontación no es más que la dialéctica de los contrarios cosa que aquí no se produce en realidad es una estrategia de expansión sindical aderezada con algunas modalidades de afirmación nacional pero no es en puridad una confrontación porque la confrontación

de la lengua es careo entre dos personas enfrentar

llamada de confrontación nota al margen tampoco concuerda que diga que vamos mejorando esto lo decía el dos de octubre

decía que todavía no habíamos tocado fondo con la crisis luego

no concuerda que digan que son partidarios del diálogo social y a día de hoy sigan sin convocar la mesa de diálogo tras haber incumplido el mandato del cinco de mayo y hasta el momento tampoco haber cumplido el compromiso

los san fermines y no concuerda tampoco

entre su partido el partido nacionalista vasco y nuestro partido el partido socialista de euskadi que en lo referente a impulsar la economía productiva y la creación de empleo plantea el impulso por parte del gobierno vasco de las iniciativas necesarias al objeto de que patronal y sindicatos alcancen acuerdos sobre la negociación colectiva en euskadi

que se hayan dado pasos en esa dirección y recordar también el primero de los principios compartidos en el acuerdo sobre la reactivación de la economía y el empleo el objetivo de una euskadi económicamente fuerte y socialmente cohesionada

deben de ser también un compromiso de los agentes económicos y sociales

hoy aquí y ahora señor consejero recordando compromisos parlamentarios compromisos de gobierno y compromisos de partido por eso le interpelamos y le preguntamos cuáles son los propósitos del ejecutivo respecto a la convocatoria de la mesa de diálogo social en relación a los compromisos

efectivamente no es la primera vez que hablamos de esta

en esta cámara hemos contestado a preguntas por escrito a preguntas para su respuesta en pleno a interpelaciones en febrero

claudicado ni hemos entrado en la estrategia de confrontación le voy a trasladar una cosa señor itxaso para que quede clara la estrategia del sindicato

y la de este consejero están en las antípodas

se ha empeñado hasta el siete de julio en buscar un acuerdo en el que nunca nunca nunca iba a estar ela

y este consejero en cuanto a estrategia están

se nos vuelve a plantear la cuestión y la respuesta sigue siendo la misma

queremos el diálogo social y queremos convocarlo cuando esa convocatoria esté justificada

de que sirva para algo si yo supiera señor itxaso que hay una conexión directa entre la creación de empleo

no tenga ninguna duda me dedicaría desde la mañana a la noche desde hoy

pero sinceramente creo que eso no es así

ese tipo de manifestaciones en un tema de tanto calado en un tema que afecta a tantas miles y miles de familias con tantos dramas humanos

otro tipo de calificaciones por nuestra parte que estoy seguro que usted también comparte dijimos el pasado mes de junio que nuestra intención

estaría pasado el siete de julio viendo qué ocurría el siete de julio en la confianza de que en ese siete de julio o antes de ese siete de julio hubieran podido las partes llegar a un acuerdo esa era una perspectiva que teníamos y que

en cierta medida esa recuperación de la confianza necesaria para poder dar ese siguiente paso que es el de la mesa de diálogo social

que posibilitara la recuperación de la negociación colectiva por un lado y

expliqué en aquel momento que dicha mesa no había sido convocada hasta entonces porque a nuestro juicio no se daban las condiciones necesarias y que la convocaríamos cuando estas se dieran

en aquel proceso negociador que se truncó en el último momento se perdió una gran oportunidad

nadie me va a quitar eso de la cabeza se perdió una gran oportunidad antes del siete de julio pues bien rota la posibilidad de conseguir el mencionado acuerdo en estos momentos por desgracia

creemos que la situación es más difícil todavía esto no ha supuesto un abandono de nuestras responsabilidades en el sentido de

de hecho tanto en materia de trabajo como de protección social salud laboral políticas activas y empleo están activos diversos foros donde los agentes sociales

e impulsan las correspondientes iniciativas como he venido reiterando en esta cámara desde el comienzo de la legislatura si hemos apostado por algo ha sido por fomentar

entre agentes empresarios y sindicatos por un bien común que es la empresa y lo hemos hecho desde la convicción de que el acuerdo sobre ese proyecto común

ante los que nos estamos encontrando en la coyuntura actual un acuerdo que supere también las incertidumbres generadas por la reforma del mercado de trabajo

un marco específico de diálogo y de acuerdo entre los agentes sociales el departamento de empleo y políticas sociales el propio lehendakari se involucró en la consecución de un acuerdo interprofesional

colectiva en el ámbito de esta comunidad diera también estabilidad a la negociación colectiva en uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral

lo que como sobradamente es conocido no fructificó este hecho unido a la desconfianza que ya existía entre los agentes sociales ha generado una situación tal que resulta

en este momento convocar una reunión de la mesa de diálogo social no lo décimos porque sí es algo que señor itxaso

en estos momentos en las reuniones bilaterales que estamos manteniendo que hemos mantenido y que vamos a seguir manteniendo

la misma semana que viene con los agentes sociales para intentar recomponer el diálogo

que no es el momento en estas conversaciones que hemos iniciado con algunas organizaciones y que todavía no alcanzan a todos los agentes hemos encontrado en algunos casos posturas favorables a un marco de diálogo

no favorables por lo tanto convocar una mesa de diálogo social

que a priori pudiera estar condenada al fracaso y creame no me estoy refiriendo a ela creemos que no es lo que deberíamos hacer pudiera resultar un mero ejercicio de imagen

podría evitarme esta sucesión de preguntas e interpelaciones convocando la mesa incluso disponiendo del dinero de la financiación que supone o que suponía

el escenario resultante sería el previsible primero expectación segundo la expectación en torno a la propia reunión de la mesa y finalmente la constatación de que no se dan las condiciones es decir la imagen de un fracaso fracaso de todos yo le adelanto la conclusión de todo ello sin tener que convocar la mesa

creame sería una falta de responsabilidad por mi parte para establecer un diálogo social real es necesario contar con la voluntad de las partes legitimadas para ello y lo que ellas nos están manifestando es que no se dan esas condiciones no hemos tenido ninguna petición

más que la que proviene de ese grupo para que constituyamos esa mesa de diálogo social no obstante puedo comprometerme

a que no vamos a escatimar esfuerzos para seguir intentando buscar puntos de encuentro soy el primer interesado en que esa mesa de diálogo social

he trasladado a los agentes sociales incluso cuál creo que podría ser parte del contenido de discusión y debate de esa mesa diálogo social lo importante señor itxaso es llegar a acuerdos tenemos que empeñarnos en ello desde la responsabilidad que como gobierno hemos asumido en este campo no nos duele en prendas en plantear diversas alternativas

contestadas públicamente por algunos de los agentes sociales a quien van dirigidas la mesa de diálogo social no es un hito

con la ilusión de que la mera convocatoria de la misma va a solucionar la casi total ausencia de relaciones laborales

y mucho menos esa relación directa con el empleo la convocatoria de esa mesa en su caso

cuando a nuestro juicio entre los interlocutores sociales se den esas condiciones mínimas que

todas las semanas por lo tanto hay reuniones bilaterales seguimos con ese trabajo señor itxaso

le pediría que nos dé tiempo le pediría que no podemos un

le pediría que si usted y yo creemos en el diálogo social como creo que así es busquemos entre todos las condiciones adecuadas

efectivo sea algo más que una imagen una fotografía de encuentro o mejor dicho de desencuentro muchas gracias eskerrik asko aburto jauna

con profusión y que este grupo se ha caracterizado por instar al gobierno a promover la mesa a abrir sus contenidos y ponerle en funcionamiento y lo seguiremos haciendo porque entendemos que es un marco

las posibles soluciones no mágicas pero

aparte de los problemas nosotros no creemos en la mesa de diálogo social como un tótem y tabú que lo resuelve todo ni pensamos que sea fetiche agitar como una bandera propagandística porque no mesa de diálogo social para empezar ni siquiera garantiza ni asegura los acuerdos como resultado

donde exponer planteamientos puntos de vista parte económica parte social y nosotros creemos que el verdadero fracaso

paraliza nuestra potencia y nos hace desistir precisamente por miedo al fracaso y yo comprendo que desde la responsabilidad de un gobierno

hay que evitarlo evidentemente hay que evitarlo pero yo quiero recordarle que el gobierno anterior que fue objeto también de muchas críticas

llevó adelante con determinación esa convocatoria que es verdad que estaba

porque efectivamente lo suyo lo ideal sería que todas las fuerzas

estuvieran presentes pero era sabido que eso no iba a poder ser porque es conocida la determinación de ela y de lab en este caso y entonces eso no impidió

aquella convocatoria y a lo mejor no surgieron grandes acuerdos pero surgieron algunos

planes de formación medidas anticrisis porque claro igual a la espera de los grandes acuerdos

y es que además es una maquinaria que si se pone a andar pues probablemente

y me refiero a la mesa de diálogo social como al consejo de relaciones laborales que hoy mismo pedía su presidente un llamamiento para que se active porque es vamos hacia una alta conflictividad una judicialización creciente

para atacar ese objetivo las condiciones ideales rara vez se producen y rara vez hay una conjunción astral que lo bendiga todo normalmente el gobernante tiene que lidiar con situaciones adversas

porque el fin perseguido está por encima del miedo al fracaso y sobre todo de un miedo al fracaso que es pura escenografía porque

y sabiendo que busca y persigue un fin socialmente aceptable y deseable por otra parte las reticencias acerca de la fuerte presencia importancia que tienen estos sindicatos que están planteando este bloqueo

está logrando su propósito de paralizar y bloquear estos órganos de encuentro

yo no dudo para nada de usted ni de su gobierno de que están poniendo toda la carne en el asador no lo dudo yo no hago crítica a

sus propósitos y al trabajo que desempeñan lo que digo es que a día de hoy esto no está ocurriendo y por lo tanto les animamos a que cojan brío a que cojan empuje y tiren para adelante por encima de todo

tendrá que salir igual igual y tendrá que remar eskerrik asko itxaso jauna aburto jauna zurea da hitza

hay que remar y lo tenemos que hacer entre todos y yo espero que en un tiempo no lejano podamos estar hablando de otras cosas

quiero ponerla en valor creo que fue positivo el que participaran en aquella mesa de diálogo social pero creo que hay que insistir

renunciar a ello en aquel momento también la mesa de diálogo social creó tres mesas sectoriales

y otra para abordar cuestiones de políticas activas de empleo y formación que no estaban transferidas hoy día esas tres mesas sectoriales no tienen sentido porque esos foros existen dentro de lanbide en el propio consejo de administración y en las comisiones que existen en lanbide y también dentro de osalan en el propio consejo de administración

en aquellos órganos hoy día se viene haciendo en otros insisto que no exista mesa de diálogo social no quiere decir que no exista

mire yo también había traído el acuerdo firmado

impulso por parte del gobierno vasco de las iniciativas necesarias para qué al objeto de que patronal y sindicatos

usted y yo sabemos señor itxaso que eso no se hace en la mesa de diálogo social

para que los agentes que tienen que firmar la negociación colectiva sean capaces de hacerlo y en eso nos estamos empeñando creo que estamos siendo fieles cumplidores de lo que así se dice y lo vamos a seguir haciendo

estamos comprobando que esa relación bilateral estuvo apunto de dar frutos y creemos que en la situación actual puede volver a dar frutos no soy yo usted mismo se ha referido al último informe del consejo de relaciones cuya conclusión es que la negociación colectiva está estancada con el estancamiento que existe en la negociación colectiva nos han trasladado

que primero hay que volcarse en la negociación colectiva

dos líneas de trabajo una vamos a empeñarnos en la negociación colectiva como mejor antídoto contra la reforma laboral y una vez hecho eso vamos a intentar un acuerdo interprofesional que de a esa negociación colectiva la prevalencia necesaria y dos yo les he propuesto un listado de temas para trabajar

todo lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la empresa en la gestión con la transparencia en la empresa con la información

con un nuevo pacto por un nuevo modelo de relaciones laborales todo lo que tiene que ver con el proceso que estamos desarrollando para una nueva ley vasca de empleo

cómo vamos a hablar de eso si tenemos la negociación colectiva como la tenemos si no somos capaces de sentarnos en las mesas si no se están convocando si no estamos llegando a acuerdos

a día de hoy no tienen convenio no tienen convenio

tenemos que ser capaces de que se generen las condiciones necesarias para que sean capaces de recuperar la confianza mirar hacia el futuro y firmar los convenios

y si ahí se dan pasos si ahí se dan pasos seestarán estableciendo mejores condiciones poder abordar la otra cuestión que la vamos a abordar evidentemente pero la abordaremos de otra manera cuando lo realmente importante sería abordarla juntos

con una mesa absolutamente participativa en la que todas las partes implicadas puedan dar su opinión sobre ese listado de materias y otras que redunden en un mejor clima de relaciones laborales que va a redundar sin ninguna duda en crear más certidumbre

señora consejera en el consejo de administración de e i te be celebrado el pasado día veinticuatro de septiembre la directora general de e i te be

dos mil dieciséis en él no se recoge ninguna mención al terrorismo de eta para condenarlo ni al reconocimiento de las víctimas del terrorismo la señora iturbe llegó a señalar en aquel consejo que

éticas en el plan estratégico porque son cosas del pasado porque citar a eta divide porque hablar del pasado nos hace daño dijo la directora efectivamente que no se cita a eta para no dividir y añadió

e impresentable en nuestra opinión las diferentes sensibilidades vemos las postales de distintas maneras estas palabras de la señora

causaron la indignación lógica de los consejeros justos

de e i te be en fin señora consejera qué le parece a usted esto qué opinión tiene está de acuerdo con la actitud y con las explicaciones de la directora general de e i te be esto se va a corregir en el futuro de manera inminente qué es lo que piensa sobre la materia es decir

al parecer divide y sin embargo solidarizarse con un personaje como karmelo landa no y en ese mismo consejo se solidarizaron ustedes

con karmelo landa el citar a eta divide sin embargo respaldar a un dirigente de hb no ciertamente curioso y lamentable cosas que ocurren en euskadi el citar

pero apoyar a un miembro destacado e histórico de los servicios auxiliares de eta a nosotros esto nos parece ciertamente un escándalo y queremos preguntarle qué es lo que a usted como consejera le parece nosotros efectivamente hemos traído aquí esta interpelación hemos pedido la comparecencia de la directora general vamos a seguir el asunto muy de cerca a pesar de que no tenemos representantes en ese consejo porque el asunto nos preocupa y nos preocupa mucho creo que tiene que corregirse esa posición inicial numantina casi contra el sentido común que mantuvo
la directora general de e i te be queremos saber qué es lo que a usted le parece gracias eskerrik asko maneiro jauna

egunkarietan quiero dejar claro sin ningún género de duda mi firme compromiso y el del equipo que dirijo con el rechazo activo de toda expresión de violencia en especial con la ejercida por eta y con la solidaridad y acompañamiento que se debe

la memoria y reparación de las víctimas del terrorismo y de quienes hayan sufrido cualquier tipo de vulneración de derechos es un principio que rige nuestra línea de actuación

creo señor maneiro que son manifestaciones lo suficientemente diáfanas y que marcan una postura sin posibles interpretaciones o tergiversaciones

en el punto dos del orden del día figuraba el plan estratégico de e i te be y ello con la finalidad de dar a conocer las aportaciones del consejo de administración en fase de borrador

en fase de borrador entre ellas y en referencia a un texto del borrador de dicho plan estratégico sujeto de la futura polémica texto que decía así

se vive un tiempo para construir la paz para reparar y normalizar la convivencia

con el mayor respeto a los derechos humanos y a la democracia es una responsabilidad histórica para la que se precisan bases sólidas y colaboración de todo tipo de agentes

y asumir esta responsabilidad ekarpen asko izan ziren

bat borobildu nahi izan zutenak hain zuzen y entre las muchas y variadas aportaciones que hubo tres fueron los consejeros que concretamente

y es así la frase quedaría después de un largo periodo histórico de violencia se proponía a añadir

y seguía y la vulneración de derechos se vive un tiempo para construir la paz

que en este texto de este primer borrador no figuraba expresamente la mención al terrorismo de eta ni al reconocimiento a las víctimas del terrorismo baina

mantenga posturas más o menos disimuladas de blandura equidistancia o ambigüedad medida al respecto uste dut

usted manifiesta que la directora llegó a señalar que no era partidario de introducir esas directrices éticas en el plan estratégico porque son cosas del pasado entre comillas y divide entre comillas también creo que distorsionamos la intencionalidad de la directora general con los entrecomillados

eta zuhurtziaren kaltetan entiendo que el texto original

modificaciones no es equívoco pero también reconozco que a tenor de las solicitudes de modificación realizadas por varios consejeros

bigarren gai hau amaitzean erabaki zen bigarren zirriborro bat idaztea nadie puede realizar juicios de intención al respecto porque después de un contraste de opiniones

ni cierre de temas correspondía a la dirección general de e i te be valorar las diferentes aportaciones realizadas y en su caso introducirlas de la manera más oportuna

a propuesta del señor consejero señor tontxu campos granados posicionamiento del consejo de administración de e i te be sí procede

pues bien la coincidencia del debate suscitado en el punto cuatro en el mismo día y a continuación del punto dos es lo que generó la controversia

no manifestó allí su decisión de dimitir ni que lo fuera hacer desde fuentes contrastadas se manifiesta que su expresión era del tenor de que

es que la dirección general de e i te be ha actuado con rapidez y contundencia y decidió sin polemizar con nadie

su posicionamiento ético y su firme compromiso de resolver satisfactoriamente el citado punto la dirección manifestó que e i te be no se reconoce en las acusaciones de tibieza o equidistancia eta zentzu horretan

idatzitako artikulu batean argi eta garbi entiendo por lo tanto que con estas declaraciones públicas

la vulneración de los derechos humanos y la reparación de las víctimas

eta guztiz beharrezkoa da gizarteak horrela ikus eta sentitu dezan quisiera manifestar que la dirección de e i te be se ha comprometido a enmendar el texto del plan estratégico incorporando las partes significativas solicitadas por los diferentes consejeros eta ondoren legebiltzarrera dagokion batzordera

que efectivamente se modificara ese texto porque nos parecía insoportable el texto original y sobre todo

explicara como explicaba las razones por las cuales no se aceptaba la modificación del texto y por eso hemos traído este asunto efectivamente es un asunto sensible y serio y por eso lo traemos a este parlamento pero no distorsionamos nada hemos entendido bien perfectamente bien qué es lo que dijo en aquella ocasión y las razones dadas

son cosas del pasado citar a eta divide hablar del pasado nos hace daño

y recoger en ese texto algo que sea meridianamente claro que no debería ser algo tan complicado pero que parece que en euskadi sí lo es y mucho un texto

trabajando para derrotarla para deslegitimarla para apoyar a las víctimas del terrorismo eso era lo que nosotros queríamos y no queríamos tanto que la directora general del ente dijera en los medios de comunicación esto o aquello sino que ese texto pudiera modificarse y pudiera va a ser finalmente así pues efectivamente nos alegramos mucho pero insisto esas palabras esas argumentaciones ese argumentario

un error mayúsculo y eso es lo que a nosotros nos provoca

de e i te be en relación a este asunto tan serio sensible nosotros no queremos un nuevo borrador más enriquecido queremos un nuevo borrador mejor correcto que hable claro y que señale aquello que algunos consejeros reivindicaron y que creo que era de sentido común y que finalmente parece ser que va a ser aceptado en fin necesitamos por tanto instituciones decentes que no siembren dudas

al parlamento y preguntamos a la consejera sino que son aquellos que dicen las cosas que he señalado antes en relación al terrorismo que citar a eta en ese plan divide y cosas semejantes ellos son los que siembran voluntariamente dudas por lo tanto

tiene que citar a eta para rechazarla porque tal cosa no divide y e i te be debe trabajar a favor del reconocimiento de las víctimas del terrorismo efectivamente y nosotros queremos que la propia consejera puesto que hemos pedido la comparecencia diga esto mismo y se comprometa a esto mismo

del parlamento vasco si no lo hace si no rectifica nosotros pediríamos su dimisión parece ser que va a rectificar y nosotros

se confirma que no hemos distorsionado nada sino que era ella la que estaba profundamente equivocada gracias eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

nahiko nituzke en primer lugar como ya he dicho

a enmendar el texto es decir se presentó un borrador a la espera de aportaciones se recogen las aportaciones y se llevará nuevamente con las aportaciones hori alde batetik

biktimekiko la primera cuestión hace referencia a un convencimiento del firme compromiso de la directora general de e i te be maite iturbe y de todo su equipo con el inequívoco compromiso en el rechazo activo de toda expresión de violencia

con la solidaridad y el acompañamiento que se debe a todas las víctimas y aquellas personas que la han padecido

de todos ustedes porque vivimos un tiempo para construir la paz un tiempo para reparar y normalizar la convivencia entre todos

con el mayor y exquisito respeto a todos los derechos humanos y a la democracia

debe y puede continuar contribuyendo efectiva y activamente a los propósitos antes mencionados garai itxaropentsuak bizi ditugu

guztiz eta bere esku dagoela egin behar honetan eraginkor izatea que en ese sentido ya que estamos tratando de algo nuclear para el futuro de la sociedad vasca debemos por responsabilidad ante precisamente esa sociedad vasca alejarnos de cualquier tentación partidista que conduzca a confusiones nefastas o malos entendidos estériles

euskal gizarte ez liguke horrelakorik onartuko tenemos la necesidad de que en el

en relación a estos conceptos básicos y éticos en concreto en la incorporación de las partes significativas solicitadas por los diferentes consejeros cara a mejorar el texto del primer borrador biziki desio dut iñaki garcia arrizabalaga jaunaren inguruan sortutako egoera deserosoa

señora consejera hoy queremos preguntarle no es la primera vez que se le pregunta por esta

para conocer sus intenciones los propósitos de su departamento a la hora de plantear una modificación del currículum para la educación básica es algo que ya hemos conocido por los medios de comunicación informaciones apuntaron en su momento

sectores del ámbito de la educación en el país vasco

se presentó por parte de su departamento un plan para elaborar y desarrollar un nuevo currículum eso que llamaban nuevo currículum vasco como si el que tuviesemos actualmente no lo fuera y la duda que

un currículum nacionalista vasco la última modificación de los decretos curriculares de la enseñanza básica son

apenas han pasado tres años y nos gustaría conocer y preguntarle se lo han preguntado hace un rato en esta misma cámara

los motivos que le llevan nada más aterrizar en el departamento a hacer una replanteamiento de

qué análisis ha hecho su departamento qué datos tiene sobre qué sustentan

esas intenciones si de verdad como se apunta en las informaciones

se vuelven a encargar esos trabajos a quienes en su día se les encargó

a las patronales de la enseñanza privada y concertada

si efectivamente ustedes tienen claro exactamente a dónde quieren llegar o si como

en una especie de nebulosa no sabemos si para que no conozcamos exactamente el detalle de sus intenciones o realmente se han embarcado ustedes en un planteamiento sin conocer hacia dónde quieren ir qué es lo que quieren modificar

y lo que nos interesaría conocer de sus intenciones para qué una modificación curricular con qué objetivo

de qué forma qué es lo que quieren cambiar y con qué objetivo y por supuesto conocer en qué

ese empeño por volver a cambiar y convertir los diseños curriculares en un elemento de confrontación

lo que ha trascendido es que pretenden introducir hablan de acercar la existencia del pueblo vasco

a nuestra realidad socio política hablan en algún documento hay ya por ahí algún documento circulando

de trabajo se habla de marco de enseñanza propio

terminología recurrente que ya tuvimos oportunidad de conocer exactamente en qué consistía porque aquí

a quienes son promotores del currículum ese currículum que nosotros denunciamos

de carácter identitario que hicieron las ikastolas

en los tiempos de ángeles iztueta o de tontxu campos

es un conjunto de decretos con el que se establece lo que deben estudiar los alumnos se establece lo que deben estudiar qué competencias deben adquirir en cada asignatura qué niveles de competencias

o deberían alcanzar en cada etapa vienen a definir los contenidos y por eso estamos hablando

realmente importante y realmente serio nos parece que a la hora de definir los contenidos es importante que sepamos qué queremos de la educación y sobre todo

queremos reabrir los debates del pasado que nos llevaron a denunciar en esta cámara a muchos grupos el intento

sobre ideologizar la educación en el país vasco

eso desde luego nos preocupa enormemente y nos gustaría desde luego conocer si efectivamente usted descarta absolutamente volver

usted conoce perfectamente como conocemos aquí los curriculums aprobados en la etapa de tontxu campos fueron anulados

fueron anulados porque no se ajustaban a la ley nos gustaría conocer efectivamente si usted quiere embarcarse en esta

en la escuela y del empeño de utilizar la educación para

creo que nos retrotraería a debates absolutamente inconvenientes

los retos que tiene por delante nuestro sistema educativo para afrontar desde luego con las mejores garantías para los alumnos

que la iniciativa del gobierno para la elaboración y desarrollo de un nuevo marco pedagógico del currículo vasco ha suscitado un gran interés esto siempre es una buena noticia me alegro mucho por ello porque tenemos claro que todos los pasos que se den hacia la elaboración y desarrollo de un nuevo curriculum parten de la vocación de un amplio consenso

soy consciente de que se ha creado una gran expectación en torno a este proceso

porque insisto en que este departamento y este gobierno

en el consenso precisamente por ello el día dieciocho de septiembre en el mismo momento en que presentamos la tan citada propuesta

solicitamos la comparecencia ante este parlamento nire

estamos construyendo los pilares sobre los que se va a sustentar todo el trabajo posterior

la reflexión realizada llegará el momento de profundizar en los contenidos pero si queremos resolver con éxito el proceso iniciado deberemos respetar los tiempos

por las cuales se considera necesario avanzar hacia la excelencia en la educación hacia una educación de mayor calidad avanzar para construir un sistema educativo sólido

avanzar en la construcción de una cultura pedagógica compartida y por supuesto intentando responder a su pregunta expondré también los propósitos del departamento en relación con la elaboración y desarrollo del currículo vasco euskal hezkuntzak egindako bidea goraipatzeko modukoa da hiru hamarkada luzeetan

guzti hori hezkuntza arloko adostasun zabal baten gainean dago eraikia pero siempre hay margen de mejora no debemos caer en el conformismo

de la excelencia en la educación la comunidad educativa a planteado en numerosas ocasiones la necesidad de consolidar un sistema que garantice la mejora educativa

pretende dar respuesta a los objetivos e iniciativas educativas presentadas en el programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis a los compromisos adoptados por este gobierno

lehen esan dudan bezala el objetivo ocho del eje correspondiente a la excelencia motor del sistema educativo dice educativo estable ese es nuestro objetivo este es nuestro propósito señor oyarzabal el de esta consejera el del departamento que dirijo y el de este gobierno

osoko ikaskuntza legea bidelagun hartuta lo anunciamos claramente en el programa de gobierno y nos comprometimos a ello en respuesta a dicho compromiso

a los agentes educativos para trabajar hacia la excelencia

además del partir del pasado y todo lo bueno que de ello tenemos debemos tener la vista fijada en los objetivos estratégicos del marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y de la formación dos mil veinte dicho marco fundamenta en nuestra propuesta y le da la necesaria cobertura

defendemos un sistema sólido y riguroso señor oyarzabal un sistema que quede al margen de cambios políticos coyunturales un sistema flexible y solidario

por ello queremos proponer un marco estable y duradero basado en un amplio consenso efectivamente la última modificación del decreto por el que se establece el currículo

y se implanta en la comunidad autónoma del país vasco tuvo lugar en el año dos mil diez hace apenas tres años como usted bien dice pero dicha modificación no fue suficiente el planteamiento de la educación basada en competencias era novedosa en nuestra cultura pedagógica en dos mil siete

posteriormente tanto en el contexto de la comunidad autónoma del país vasco

que proporcionan mayor solidez y seguridad el decreto ciento setenta y cinco barra dos mil siete modificado en dos mil diez tiene

sin embargo hay aspectos mejorables si queremos avanzar firmemente hacia los objetivos de europa dos mil veinte helburua argia da gure asmoa zehatza da

debemos alcanzar un marco adecuado que garantice la mejora educativa y la defensa del currículo vasco frente al desarrollo normativo

que nos permita continuar avanzando hacia la excelencia en la calidad

no exento de dificultades pero estoy convencida de que con la implicación y participación

políticos y sociales conseguiremos el resultado deseado nuestro sistema educativo merece el mejor marco pedagógico

desde el entendimiento y el acuerdo confiamos en la fuerza con un amplio consenso y trabajaremos duro para conseguirlo eskerrik asko uriarte

yo le llamaría alarma no ha generado expectativa ha generado alarma no es que pueda estar encantada por el interés que ha suscitado lo que ha suscitado es preocupación

preocupación y alarma preocupación por los jardines en los que usted haya decidido adentrarse en este momento de la legislatura

lo que ha suscitado no ha concretado nos habla de que los anteriores currículos

que hay que cambiarlos no nos dice exactamente qué es lo que no sirve qué es lo que quieren introducir ahora

lo que se está trasladando de los movimientos y de los pasos que dan ustedes es que efectivamente aquí hay una vuelta de tuerca que tiene que ver mucho más con la política que realmente con las necesidades pedagógicas en este momento de nuestro sistema educativo

y si no lo hacen rápido lo que nos va a llevar es realmente sin esos argumentos contrastados a sospechar que ustedes vuelven a pretender utilizar

que es el empeño que han tenido muchos a lo largo de estos treinta y cinco años

que nosotros hemos venido denunciando y nosotros hoy queremos reivindicar aquí un sistema educativo que piense en la calidad de la enseñanza efectivamente usted lo ha señalado pero nosotros queremos reivindicar ese sistema educativo una educación en el país vasco que

que busque la excelencia que luche contra el fracaso escolar

que sea puntero en la enseñanza del inglés se lo venimos reclamando desde que usted tomó posesión

ese es uno de los principales retos de este momento que aproveche las oportunidades de las nuevas tecnologías otro de los grandes retos sobre todo queremos una educación

queremos una educación sin manipulaciones sin tergiversaciones de nuestra historia eso es fundamental también

es fundamental conocer exactamente cuál es su determinación como consejera qué impronta vamos a poder

con los agentes educativos y si realmente usted quiere abordar su mandato

la búsqueda del acuerdo en el terreno del entendimiento o si realmente usted vuelve a

los elementos de mayor confrontación que hemos vivido

que vivimos durante mucho tiempo en esta cámara una educación que busque la verdad que forme personas

crítico pero esa es la educación que queremos una educación

a los jóvenes eso es lo que queremos una educación que eduque en valores que sepa educar en el respeto a los demás

de nuestra comunidad donde se pueda poner en valor el acuerdo

división que es mejor sumar que dividir esas cosas que a veces nos empeñamos en que sean justo las contrarias en la escuela

con la escuela que tenemos y con la escuela que hemos

y eso significa que tenemos que apuntar hacia esos valores una escuela que tiene que fomentar exactamente justo los valores que más necesita esta sociedad y no trabajar en la dirección contraria no justo buscar siempre permanentemente introducir en nuestros jóvenes

como si fuesen realidades opuestas contrapuestas contradictorias y absolutamente separadas tergiversar nuestra historia manipular a los jóvenes es justo lo contrario de lo que necesita la educación en el país vasco

propuesta que se ha realizado a los agentes

quisiera trasladar un mensaje de tranquilidad repito un mensaje de tranquilidad es deseo expreso de este departamento

compartir este gran proyecto con los agentes educativos políticos y sociales y adquirimos el compromiso de no aprobar aquello que no sea objeto de consenso la alarma está en otro sitio la alarma

intencionadas que puedan darse partiendo por los medios de comunicación hemos dicho que haremos

en este parlamento ante la comisión de educación de cuál es la propuesta y tendremos nuestro tiempo para poder hablar

dagokion momentuan egingo du por eso el mismo día dieciocho

en este parlamento en la comisión de educación y esta se materializará el próximo catorce de octubre será entonces cuando se pueda avanzar acerca de las conclusiones que se deriven del proceso reflexivo llevado a cabo será entonces cuando se trate este tema en profundidad déjenos trabajar por favor

que tiene su origen en el propio programa de gobierno no hemos inventado nada ez dugu orain asmatu

que permita consolidar en la comunidad autónoma del país vasco un sistema educativo que garantice la mejora educativa